por lo tanto entendemos que hay razones de sobra para haber convocado el monográfico la importancia intrínseca de los fondos ya que estos van a condicionar de manera notable la capacidad de acometer inversiones

opaco y diría que turbulento y la importancia

dos semanas quedan solamente para que se cierre la lista de proyectos definitivos que se envía a madrid en una frase este monográfico debiera servir metafórica pero también políticamente para abrir una lata que el gobierno básicamente el pnv

la crisis de la covid ha hecho emerger un cúmulo de problemas de calado que se han venido gestando

arrastramos un modelo económico depredador del entorno que está chocando ya con los límites biofísicos del planeta una degradación de la cohesión social

una estructura productiva ajada y una ruptura unilateral del contrato por parte de las élites un desorden civilizatorio en suma que nos muestra en el espejo la disyuntiva de transformarnos o colapsar solamente una reflexión sincera y un esfuerzo conjunto nos puede poner en disposición de abordar con garantías una inaplazable metamorfosis social porque este país

entonces en lugar de pedir responsabilidades a quienes habían convertido la economía en un casino

que habían especulado por encima de sus posibilidades se nos dijo al resto que habíamos vivido por encima de las nuestras y sobre esa sentencia se rescató a los responsables

que se tradujo de inmediato en un debilitamiento de las condiciones de vida y trabajo

y de un vaciamiento de la potencia de las políticas públicas que explican en buena medida la falta de resiliencia la falta de capacidad de sufrir un golpe

daitekeena idaztera vuelve la cosa pública

que dirige vuelve a salvar la situación o al menos

con un paquete de estímulo enorme para intentar desactivar el riesgo cierto de parálisis el riesgo cierto de profunda depresión una suerte de del plan marshall de posguerra ahora

pero hay una diferencia fundamental que no conviene olvidar hoy

estamos en un mundo al límite con recursos materiales menguantes y en el que los decenios de excesos de nuestro metabolismo económico y social

como la climática que amenaza como espada de damocles a la vida

de ahí que el refuerzo de la política social anunciada la transición energética inaplazable

de empleo buscada todo en definitiva queda supeditado a los objetivos de neutralidad climática y al principio rector de no más daño al planeta política keynesiana sí se quiere sí pero inevitablemente adecuada a los límites ecológicos

batzordean esandako hitz batzuk literalki desde el pnv esperamos que los estados superen la tentación de gestionar estos fondos de manera centralizada y en solitario eta gu

gobernuarekin este proceso se podía haber tomado se podía haber hecho tomando en cuenta que efectivamente y eso no lo hemos negado era responsabilidad del gobierno entregar una lista con proyectos financiables en unas determinadas fechas

en el que todos tuviéramos la oportunidad de pensar diseñar definir recoger diferentes aportaciones y decidir clasificar y jerarquizar lo que más nos interesara esto es un marco de gobernanza colaborativa en lugar de esto ustedes han decidido básicamente hablar con ustedes mismos

en términos básicamente de partido y allegados y esa propia concepción estrecha del poder y de la gobernanza

a los lastres generados durante mucho tiempo en forma de beneficiarios habituales y equilibrios imposibles entre partes interesadas les ha llevado a hacer un proceso opaco caótico y poco eficaz una carrera de codazos

entre actores territoriales económicos sociales y políticos

se ha limitado primero a intentar adaptar los fondos a sus planes previos empezando la casa por el tejado con una lista con dos que han condicionado todo el proceso

al revés iniciar un proceso de reflexión sobre lo que se pedía después

pedir asesoría a una consultora que por cierto les avisó de que lo estaban haciendo bastante mal crear

intragubernamental hace menos de un mes hacer un puñado de reuniones y suponemos aunque no se nos ha dicho atender el desfile en la puerta de no sabemos si de lakua

y con esto piensan finiquitar el asunto y a partir de ahí ustedes aspiran a que nos conformemos con leer el plan

y a ser informados de vez en cuando de lo que van haciendo pero informar no es gobernar colaborativamente o tomando prestada la expresión de fernando alburquerque investigador asociado de orkestra

amplio diverso para primero hacer un ejercicio prospectivo de lo que queremos hacer en este momento crucial

cómo revertir en la sociedad el beneficio de este ejercicio de emprendimiento colectivo a través de la selección y priorización de lo que queremos poner en marcha y por último

crear un sistema de mejora continua y fiscalización de los resultados que se vayan obteniendo porque tal vez no todo lo que se lance con estos fondos será exitoso y habrá que rectificar y habrá que hacer seguimiento en este sentido y por poner un solo ejemplo

para la gestión de estos fondos fue la creación de una oficina antifraude de fondos europeos

nosotros qué nosotros no nos acordamos de antecedentes de proyectos supuestamente disruptivos financiados públicamente

no tenemos presente por ejemplo el recuerdo de hiriko por poner uno funtsa hauekin egindako prozesu ezberdinak aztertu ditugu eta zaila da topatzea

es demasiado como para no ser claros y contundentes se necesita una auténtica transformación material y cultural que exige un liderazgo público fuerte

así ha definido la unión europea la misión civilizatoria que supone alcanzar la neutralidad del carbono antes de dos mil cincuenta

una metáfora que nos recuerda que lo que toca es poner todas las capacidades de un país

una misión que la economía de mercado en base a las políticas que han operado en los últimos decenios es incapaz de completar y no solo es el qué

la transición ecológica para alcanzar la neutralidad de carbono lo cual ya de por sí es una tarea hercúlea sino que además se trata de hacerlo socialmente cohesionados y cohesionadas

la justicia climática y les leo un pequeño pasaje de la economista que mejor parece haber recogido

el signo de los tiempos y cito el modelo capitalista actual

el estúpido papel de arreglar los fallos del mercado y casi siempre

un sector público más ambicioso que sea capaz de cambiar el sistema económico actual para producir esos cambios lo primero es catalizar todos los sectores

necesitamos un sector público más ambicioso y que apueste por cambiar el sistema capitalista esos cambios radicales pasan por un nuevo enfoque

esta idea ya la está incorporando la unión europea y ya está trabajando en cuáles serán las misiones

de la transformación sistémica de economías sociedades y narrativas necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y abordar la emergencia climática

y por cierto es la asesora del comisario europeo de investigación e innovación aunque no saquen nada más de esta intervención quédense con esta recomendación

y por favor léanlo porque esta y no otra es la visión que subyace en los distintos programas que está lanzando la unión europea incluido

y esto es así porque la situación de emergencia social y climática no deja otra opción que apostar por cambios profundos en las políticas económicas

recomendamos la lectura también a usted señor lehendakari ausente y a su gobierno porque ustedes no caminan en esta dirección en aspectos fundamentales

que no se puede llamar desarrollo humano sostenible por mucho que hayan incorporado la terminología

pero la práctica no ha llegado la política energético climática es buena muestra de ello y los resultados conocidos la política de infraestructuras tres cuartos de lo mismo en el campo tecnológico decisiones estratégicas erróneas como la venta de euskaltel el desmantelamiento del sector tecnológico el adelgazamiento del sector público

el desprecio a la economía circular que incluye inauguraciones de incineradoras en emergencia climática

a los residuos industriales que ha traído lo que ha traído o la falta de planificación e inversiones

a la crisis de los cuidados ese ha sido el sello pero resulta que las políticas económicas liberales neoliberales ya no se llevan nos han traído al borde mismo del abismo han resultado nocivas en términos ecológicos

inclusivo y euskaltel es un ejemplo paradigmático de fracaso en términos sociales resulta que nos hemos desprendido de la infraestructura pública de banda ancha

una infraestructura pública estratégica sobre la que ya no tenemos control público y social hacer esto

es muestra irrefutable de la falta de visión estratégica que ha imperado en los últimos años e insisto en el giro que viene

en política económica el sector público no está como se ha intentado señalar para generar las condiciones de contorno para que después el capital privado se disponga a dar respuesta a necesidades sociales no porque esto ha demostrado ser un desastre en términos sociales y ecológicos

debe jugar un papel emprendedor proactivo e intervenir en la configuración social y económica la participación en la financiación de un proyecto estratégico

de la participación en el capital social de forma que el sector público puede ejercer un rol activo y emprendedor en aquellos sectores económicos estratégicos

lo son porque de no hacerlo terminaremos impulsando proyectos que respondan a necesidades corporativas particulares más que al interés general la inversión

determinará la orientación del desarrollo económico y social de nuestro país en la siguiente década

en términos civilizatorios pero también queremos resaltar que nuestra posición relativa en el entramado productivo internacional pasa precisamente

el empecinamiento en un modelo de desarrollo caduco lastrará la capacidad del tejido productivo vasco

porque estamos y estaremos en un contexto de escasez de recursos y a la vez

a repensar las prioridades de actuación y la asignación de recursos sobre los principios de generación de riqueza y reducción de las desigualdades sociales con un planteamiento audaz aplicar las teorías del presupuesto base cero

y focalizar allí la asignación de recursos para realizar la gestión más eficaz y eficiente en este entorno de alarmante escasez a tenor de la primera y segunda lista de proyectos y de next euskadi que es sobre lo que podemos hablar una de dos

o están impedidos de hacer un planteamiento que se ajuste a las orientaciones europeas lejos de fijarse las experiencias europeas punteras y ver

para una gran modernización de nuestro país el primer reflejo de su gobierno fue el que fue intentar pivotar el grueso de las opciones que se abrían

y muchos más proyectos bajo la misma lógica hasta tal punto que la propia consultora que contrataron para evaluar lo que se proponía les dijo esto no cuadra con lo que se está buscando en europa y me dirán que la lista ha cambiado pero tampoco tendremos acceso al contenido

obligados a hablar de lo que hemos visto lo que está en juego en resumen termino es hacer de este país el territorio climáticamente con menos desigualdades sociales de europa y esto solo se puede hacer entre todos y todas hay buenas pistas eslovenia y la economía circular

los países más avanzados caminan ya en esas direcciones hay que girar el volante y tomar el rumbo adecuado sin más demora hau

sería en mi opinión dice un error limitarse a tratar de recuperar el crecimiento económico anterior el cual incorpora muchos de los componentes que explican los orígenes de estas pandemias iraganaren nostalgiak

buenos días señoras señores parlamentarios este es un pleno de máximo interés en el que vamos a tratar temas críticos para el futuro del país vasco pero llega en un momento extraño y que muy probablemente va a morir mañana mismo con la presentación del proyecto de presupuestos generales para nuestra comunidad autónoma de cara al próximo año llegamos a este punto al debate acerca de los fondos europeos para la recuperación tras los estragos causados por la crisis sanitaria

el señor azpiazu asegurando en comisión de hacienda que prácticamente

que poco hay más que vagas ideas e inconcreciones pero me van a permitir que ponga en duda dichas afirmaciones que dé por hecho que el pnv lleva tiempo negociando con moncloa su particular cupo con cifras si no exactas sí muy aproximadas

suficiente y de mucho calado para realizar este debate en este momento

seguramente porque prefieren las negociaciones a puerta cerrada y a oscuras para que nadie sepa qué es exactamente lo que están tramando

dos cuestiones que están fuera de toda duda y que tienen una muy difícil réplica dos decisiones que denotan las verdaderas intenciones de pnv de este ejecutivo la urgencia con la que en agosto pasado se contrataron los servicios de pricewaterhouse

y por otro lado la creación de una comisión interdepartamental el pasado veintisiete de octubre y su constitución el diecisiete de noviembre así las cosas es evidente que ya está lanzado el proceso de diseño y de elección de proyectos financiables con dichos fondos y el posible reparto de caudales

la nula participación del tejido económico en el diseño de iniciativas y no me refiero solo a las patronales sino especialmente a las propias empresas las principales paganas de esta crisis y la forma sigilosa absolutamente opaca

son dos razones de mucho peso para que en vox desconfiemos de sus intenciones para que no veamos con buenos ojos las gestiones que están realizando y el modo en que las están haciendo cuando está en juego la obtención de fondos que deberían servir para modernizar la economía vasca y la economía española que deberían convertirse en un elemento tractor del futuro modelo económico del país vasco además

es muy preocupante que tanto ustedes como el señor sánchez estén dispuestos a trocear en dieciocho pedazos

ayudas llamadas a modernizar la economía de un país españa

una crisis sanitaria económica social e incluso de modelo de convivencia

y aceptado por su socio el pnv la apuesta serán diecisiete modelos económicos diferentes una carrera cuya única meta es el despilfarro y el pillaje pero vamos a entrar en materia que sobre el tapete se han puesto ya cifras que aunque no parecen definitivas

de acuerdo a las últimas estimaciones oficiales españa va a recibir del mecanismo para la recuperación y la resiliencia significativas cantidades de dinero en subvenciones a fondo perdido a saber cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta millónes de euros en los dos próximos años

cifras muy concretas que prometen ser algo más que una estimación y en ambos casos cantidades de dinero muy importantes para españa y para cada una de las comunidades autónomas además se calcula que nuestro país españa recibirá de los fondos de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de europa

para su ejecución en los dos próximos ejercicios una prueba más

ahora bien y volviendo la vista atrás es importante tener en cuenta que para el aprovechamiento de estas subvenciones a fondo perdido el gobierno de españa debe preparar un plan nacional

en el marco del mecanismo para la recuperación y resiliencia por este motivo el gobierno de la nación está elaborando el plan español de recuperación transformación y resiliencia el cual deberá ser remitido a la comisión

un plan con un conjunto de proyectos de inversión y reformas estructurales

un borrador del plan en cuestión y el borrador del correspondiente plan presupuestario como todos ustedes saben está prevista la activa participación de las comunidades autónomas en la cogobernaba del proceso

con la constitución de una conferencia sectorial para su ejecución además las comunidades autónomas también tendrán una participación activa en la gestión de los fondos disponibles a través de la firma de convenios con los ministerios competentes

también las empresas y representantes de la sociedad civil podrán presentar proyectos para ser financiados por el plan nacional de recuperación y resiliencia

dependiendo de temas y sectores y así llego a lo que atañe de forma más directa al país vasco a esas inconcreciones a las que aludía en comisión el consejero de hacienda pero que son bastante concretas a poco que se revisen algunos datos oficiales

para la renovación y reactivación económica y para la creación de empleo en el país vasco posteriormente se creó el programa de recuperación y resiliencia de euskadi

el programa marco de crecimiento sostenible y empleo que integra a ambos cuenta con una estimación presupuestaria de trece mil trescientos millónes de euros para el periodo dos mil veinte dos mil veinticuatro de ellos nueve mil seiscientos millónes corresponden a los dos grandes ejes de reactivación económica y creación de empleo

en conceptos de avales a empresas y a personas autónomas y aún podemos concretar algo más el presupuesto total los referidos nueve mil seiscientos millónes se distribuyen así siete mil novecientos treinta millónes para el eje de reactivación económica

seguimos con los detalles de eso que el gobierno nos presenta como bruma como borradores como algo difuso y etéreo el eje uno el de reactivación económica se despliega en seis grandes ámbitos dan cabida además a las líneas o vectores estratégicos a desarrollar para contribuir a la reactivación económica en el marco programa

para infraestructuras públicas y transformación de la educación y sistema sanitario

un treinta y cinco coma cuatro por ciento del total a investigación

el treinta y uno coma cuatro por ciento para transición energética y medioambiental trescientos setenta y cinco millónes de euros el cuatro coma siete por ciento los fondos previstos para industrias y pymes servicios avanzados industrias creativas e internacionalización

el dieciséis coma dos del total la industria alimentaria dispondría de seiscientos treinta y seis millónes

y cultura industria del turismo y cultura se prevé que se beneficien de trescientos cuarenta millónes un cuatro coma tres por ciento

especialmente los porcentajes la primera conclusión es obvia los proyectos en infraestructuras son los que acaparan un mayor volumen de fondos el treinta y ocho por ciento de los previstos

mientras que el sector terciario el más castigado por la crisis económica solo recibirá el quince por ciento de dichos fondos es decir menos que agricultura

y ténganse en cuenta que esta representa el veintiuno por ciento del producto interior bruto del país vasco y que la agricultura supone cero coma siete por ciento de este pib y los servicios excluida la parte pública

por ciento sus datos que carecen de la más elemental lógica y que discriminan a un sector con respecto a otro precisamente al que

en el buen camino el objetivo principal del fondo de recuperación next generation es afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis del covid diecinueve

ni el túnel entre ambas márgenes de la ría de bilbao han sufrido de una forma especial de manera especialmente significativa

y en esta misma línea permítanme una observación acerca del reparto territorial de las grandes obras de infraestructura que se pretenden financiar prácticamente todas

dejando para otros tiempos muchas de las que se deben realizar en álava y gipuzkoa

ha azotado a todas y cada una de las provincias vascas muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen

muchas gracias señora presidenta miembros de la mesa miembros del gobierno señorías el pleno que no reúne

a la definición de la orientación estratégica y de los proyectos prioritarios de la comunidad autónoma vasca en el marco de los fondos europeos para la recuperación proyectos conocidos y amparados en lo que será el fondo next generation europa en primer lugar

hoy es un día para reivindicar el proyecto europeo la vigencia del proyecto europeo hay aquí en esta cámara algunos partidos sentados

naciones o misiones y sobre todo en la integración que tienen en los grupos los diferentes grupos que integran el parlamento europeo europa ha salvado a españa en muchas ocasiones la salvó

la salvó con dándole un marco de estabilidad

de la crisis económica y financiera reciente que se ha sufrido y la está volviendo a salvar ahora no solamente con este tipo de iniciativas

europa es hoy el freno a las tentaciones populistas de muchos gobiernos entre ellos hay que decirlo también el gobierno español una vez más se demuestra también la necesidad de una mayor y mejor gobernanza económica a nivel europeo que esté basada en la coordinación en la transparencia en la solidaridad y en la visión de futuro

pero europa no es y no puede ser un cajero automático los fondos europeos objeto de este debate tienen que estar condicionados y están de hecho condicionados a la realización de una serie de reformas estructurales reformas estructurales importantes a nivel nacional y a nivel autonómico estamos oyendo hablar en este parlamento desde hace un tiempo de la manera en la que se van a gastar los fondos de la manera en la que se van a seleccionar proyectos etcétera eso está bien ese debate tiene que ir acompañado también con el debate sobre las reformas importantísimas reformas estructurales que hay que realizar en el ámbito nacional y también en el ámbito autonómico porque hay una cuestión que parece olvidarse muchas veces por parte de algunos grupos de esta cámara y es que euskadi se beneficia de la integración europea evidentemente y se beneficia de la pertenencia

y aquí es muy necesario reivindicar también los elementos de coordinación entre los gobiernos nacionales y en este caso también los gobiernos regionales estos fondos europeos

unos procedimientos de endeudamiento específicos europeos que será una deuda que tendrán que pagar la siguiente generación es una deuda que va a tener que pagar la siguiente generación y por eso esta la actual tenemos la responsabilidad de realizar las reformas necesarias

pueda disfrutar del bienestar del que también nosotros hemos disfrutado

pues mire el mecanismo europeo que imagino que luego el consejero cuando tome la palabra el gobierno nos lo explicará pero esencialmente este mecanismo de ayudas

está integrado por tres elementos fundamentales hay un programa que es el mecanismo de recuperación y resiliencia hay otro programa más específico que también está dotado con una serie de prestamos y demás bonificaciones

destinado a reforzar algunos programas del presupuesto veintiuno veintisiete porque hay que tener en cuenta una cuestión y es que

es importante la cuestión presupuestaria porque se desarrolla siempre en marcos plurianuales es decir el marco de previsión presupuestaria a nivel europeo

con base en esa planificación plurianual en distintos años es la base con la cual hay que desarrollar todos los proyectos y todas las actuaciones en el ámbito nacional

con unos criterios generales que ya más o menos conocemos pero también con los criterios específicos que se establecen en el semestre europeo y con la agenda digital verde no hay que olvidar que europa viene siendo una entidad internacional que ha defendido y defiende como nadie el aspecto también de la transición a las nuevas energías y sobre todo también el aspecto verde que forma parte de lo que se entiende como el modelo económico europeo la economía social de mercado y el propio ordoliberalismo del que en esta cámara pues se ve que

plenamente comprometida con el aspecto también digital y sobre todo verde

nos encontramos en un momento en el que hay que definir los proyectos específicos

escoger directamente o seleccionar cuáles son esos proyectos y las comunidades autónomas han desarrollado distintos procedimientos y aquí es una crítica que sí que me gustaría dejar patente en esta tribuna

hay comunidades autónomas que desde el primer momento establecieron o había una comisión específica o bien en sede parlamentaria y demás para contribuir a diseñar una metodología para seleccionar qué proyectos iban a ser finalmente elegidos eso es una cosa que no hemos hecho en euskadi el propio consejero lo reconoció el otro día en su comparecencia

esto no es una financiación para la financiación sin más de gasto corriente aquí hay una va a haber una evaluación y solamente los proyectos que sean positivamente evaluados

tendrán financiación que será distribuida por la comisión europea a medida que se vayan cumpliendo los objetivos y la comisión europea puede suspender la transferencia

en casos de deficiencias en la ejecución o incluso en casos de incumplimiento de las reglas fiscales el tema de la regla de gasto deuda etcétera o también en supuestos incumplimientos de deficiencias en lo que se llama el estado de derecho todas estas reformas es otra cuestión muy importante hay que implementarlas en un plazo máximo de cuatro años desde la aprobación y las inversiones se permite como sabe hasta siete años por tanto ese es el calendario

entendernos en este contexto españa va a ser el segundo país que más dinero va a recibir justo después de italia y una cantidad relativamente similar

directas por parte de la unión y luego habrá otras cantidades que será

lo importante de esta cifra y lo que tenemos que tener todos en cuenta es lo siguiente mire el dinero que venga de europa no puede ser un dinero que sufrague solamente o que sufrague gasto corriente y gasto estructural es decir

proyectos que contribuyan a la dinamización de la economía

esas reformas estructurales tan importantes que durante tanto tiempo en españa

paradas y nunca ha sido un buen momento pues bien este es ya el momento de realizar esas reformas sobre esta cuestión hay que decir que

la comisión europea le ha dado nos ha dado una serie de indicaciones qué se nos pide desde europa qué nos pide el semestre europeo pues mire es muy importante mantener un control sobre el crecimiento del gasto y aquí hay una serie de cuestiones que no son competencias de este parlamento pero que hay que tenerlas claras

quizá sí en el ámbito autonómico pero la reforma de las pensiones una mejor gobernanza en la contratación pública invertir en innovación y transición energética asegurar la unidad de mercado en españa hemos todo lo posible por evitar la unidad de mercado lo venimos demostrando siempre cuando se aprueba una ley sobre unidad de mercado

que por cierto fue recurrida por el gobierno vasco y que finalmente el constitucional

con los deseos en este caso del gobierno vasco pero que en todo caso ha sido

en último lugar también es muy importante el aspecto relativo a la mejora de los servicios sociales y del empleo la mejora de los servicios sociales y del empleo entre ellos los servicios de empleo como tales yo creo que esta es una cuestión que tiene margen de mejora en el ámbito vasco

armonización de servicios sociales etcétera etcétera como decía ya es hora de realizar las reformas también como decía uno de los padres fundadores de la unión europea jean monnet que seguro que lo conocen todos ustedes

cuando están resignadas por la necesidad y solo ven necesidad en períodos de crisis pues bien esta es la crisis y este es el tiempo de cambio qué reformas deberíamos implementar en qué reformas debería gastarse el dinero españa y en qué reformas debería gastarse también el dinero nuestra comunidad autónoma

en segundo lugar habría que transformar españa y las regiones españolas y las comunidades autónomas

hay que aprovechar también la transición ecológica en tercer lugar para liderar la economía verde devolver a nuestra sanidad a su posición de liderazgo mundial

y transparente en esto es en lo que deberíamos invertir y digo invertir ese dinero que va a venir de la unión europea y españa

por qué no se va en una buena dirección en primer lugar porque no hay un plan el gobierno

ha incluido los fondos europeos en esos presupuestos es verdad que el gobierno vasco

incluido en el presupuesto pero sí que es cierto que para discutir este tema tendríamos que analizar también en profundidad el presupuesto por eso sí que es cierto que

los distintos consejeros presenten las partidas presupuestarias en la comisión de economía

en segundo lugar porque tampoco hay expertos en el ámbito nacional y en el ámbito de euskadi hay que hacer una crítica en este sentido también el modelo de gestión se basa en círculos participativos informales que van a debatir propuestas etcétera negociaciones con gobiernos autonómicos así no se seleccionan proyectos que vayan a ser competitivos que vayan a ser tractores que vayan a ser realmente eficientes y que vayan a realizar

las reformas necesarias que este país necesita hay que destacar la extremada politización de todo este proceso politización porque

pero de la mía nosotros lo que defendemos es un modelo alternativo que es el modelo europeo que es decidir los proyectos de acuerdo con unos procedimientos abiertos competitivos

cuáles son los mejores estos fondos van a ser o van a suponer una cantidad grande de fondos muchos fondos para gastar rápido para gastar rápido y españa aquí viene demostrando en el caso de euskadi un poquito más atenuadamente pero también es partícipe de esta singularidad

en gastar los fondos europeos tarda bastante en gastarlos siempre a última hora y siempre a última hora con proyectos o de una forma demasiado acelerada y que luego a veces también escapa a ciertos controles por lo menos parlamentarios lo que no puede ser es que esto se convierta en otro plan e de zapatero hay que realizar un

un control y sobre todo un seguimiento de lo que tiene que ser la ejecución de estos proyectos cuál es la situación específicamente que tenemos en euskadi pues mire desde que se empezó a hablar de estos fondos de reconstrucción

al gobierno vasco de muchas maneras y por parte de muchos grupos de la cámara que estableciese un criterio que declarase de qué forma se iba a gastar se iban a emplear estos fondos en euskadi el gobierno

primero se dijo que el parlamento estaba disuelto por tanto verá ahí tenemos una diputación permanente que muy bien podría haber

que es lo que tiene que hacer y que es lo que es estatutaria y constitucionalmente

representación de la cámara en este sentido para las cuestiones urgentes mientras el parlamento está disuelto después de esto se encargó a una consultora

un listado de posibles proyectos que tampoco sabemos en qué va a quedar tampoco sabemos en qué va a quedar esos proyectos se enviarían al gobierno español para

que luego podrían contar o no con la financiación europea

don pedro maría aquí presente con nosotros tampoco dio muchas explicaciones sobre el método o la sistemática para elegir los proyectos

no dio tampoco o no destacó cuál va a ser la metodología específica yo le recuerdo

de mi grupo y a título personal y es la falta de una comisión especializada en este parlamento que controlase la aplicación de los fondos la falta de una metodología de selección de los proyectos la falta de un listado o de un calendario de reformas específicas que son las que nos está demandando europa ya discutiremos esto más adelante

el presupuesto que nos va a mandar tiene que estar también en consonancia con un calendario específico de reformas vuelvo a insistir en esto es un presupuesto según nos hemos enterado por los medios de comunicación con importantes incrementos

a la amortización de la deuda es un incremento importante pero todavía faltan explicaciones y sobre todo esto ya lo comentaremos insisto pero también es necesario sean unos presupuestos realistas porque las previsiones de crecimiento que está manejando el gobierno vasco distan un poco de la que están haciendo

como también otras autoridades u otras instituciones privadas qué conclusiones cabe extraer de esta

sobre todo este proceso de manera constructiva pero hay que decir las cosas claras en primer lugar la actuación del gobierno español y la actuación los gobiernos autonómicos que en este caso

con el gobierno español y se relaciona políticamente

y en el nuestro en concreto además son socios de gobierno pues sí que hay una sintonía se reconoce que hay una sintonía con las que sean prioridades europeas lo que pasa que una cosa es que haya una sintonía por así decirlo

etcétera infraestructuras sostenibles pero otra cosa ya es verlo

es muy importante tener en cuenta que estos fondos no son para nosotros estos son los fondos de la siguiente generación estos son los fondos que nos va a tocar a nosotros administrar pero la siguiente generación de ahí la responsabilidad de los que estamos aquí hoy

para asegurar el futuro de la sociedad en segundo lugar lo que destaca absolutamente es la absoluta falta de un calendario

y de las que también se puede beneficiar y se beneficiaría lógicamente euskadi el plan que el gobierno ha enviado a bruselas pues no hace mención

simplificando mucho en materia de educación de empleo de innovación retos demográficos sistema sanitario o el estado del bienestar esta es una oportunidad histórica la que tenemos aquí ahora es una oportunidad histórica para hacer las reformas esenciales

un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo sin embargo el plan que ha enviado el gobierno nacional y entendemos por tanto que

la verdad es que está destinado a seguir financiando el gasto corriente no solo financiando el gasto corriente sino que es que el gobierno español ha incluido las previsiones

hombre esto dista mucho de ser yo creo que una gestión

eficiente de los fondos existe el riesgo espero equivocarme pero

un riesgo cierto de que estas inversiones acaben convirtiéndose en gastos estructurales en gastos permanentes recurrentes

las reformas que son necesarias en tercer lugar hay que destacar también que hasta el momento la forma en la que se están gestionando

a recibir estos fondos viene siendo un gasto politizado y sin mecanismos de control esta es otra de las profundas deficiencias del plan que es

el grandísimo control político de los fondos y que no haya que no se prevea una agencia independiente que supervise y evalúe que supervise y evalúe estos proyectos y estos gastos ya nos pasó anteriormente cuando hubo que hacer las reformas

con la actualización en españa de nuestro sistema fiscal que

tiene toda la pinta de que nos van a volver a obligar ojalá nos obliguen porque será la manera de tener una autoridad realmente independiente transparente y que realice una fiscalización adecuada de estos gastos y de estos proyectos preocupa mucho esa excesiva centralización

tampoco entiendo muy bien qué quiere decir pero luego eso sí la decisión política última

los foros de alto nivel que se han anunciado no tienen capacidad real para influir en las decisiones y no van a estar compuestos por expertos sino por representantes sectoriales

la manera más eficiente de gastar el dinero público tiene que pasar por

de expertos otro problema serio que tiene españa y que vienen teniendo las administraciones españolas

en la absorción de estos fondos es decir la falta de capacidad para gastar de manera eficiente siempre se acaba gastando casi todo al final los procesos de ejecución van muy poquito a poco y ya al final cuando te dicen que o te lo gastas o lo devuelves

en cuarto lugar hay que destacar que las cifras que viene dando el gobierno el gobierno español el gobierno vasco entiendo que está también a la expectativa de esto pero

poco creíbles digo poco creíbles por esa inclusión directa que se hace

en los próximos presupuestos no está claro que esto sea una posibilidad y sobre todo

de lo que es la esencia de este tipo

condicionados a la consecución de una serie de objetivos al margen de lo que es el gasto ordinario en segundo lugar el gobierno y en esto el gobierno vasco también tiene su parte de culpa el gobierno ha presentado una estimación de déficit muy poco realista y lo vuelvo a repetir el gobierno vasco también tiene unas previsiones de déficit que hombre son propias tienen su propia metodología la airef ya les pidió unas aclaraciones pero ni la airef

no plantean un crecimiento en este caso tan alto como el que plantean ustedes y en cuestión de déficit

hay que mirar en estos casos hay que ir con la verdad por delante y sobre todo hay que establecer estimaciones que sean realistas

y por último bueno y esto sobre todo en el ámbito nacional pero aquí no me extrañaría que pasara en breve pues estas promesas que de repente se van a crear no sé cuántos puestos de trabajo no un millón ochocientos mil puestos de trabajo tampoco parece que esta sea la manera de gestionar

que estos fondos también incluyen la cláusula del estado de derecho es decir que los estados se comprometen a respetar la esencia de lo que son las bases del estado de derecho

en su ámbito y aquí es muy importante que recordemos muy importante que tengamos en cuenta

en la materia o relativo a la forma de seleccionar al consejo general del poder judicial a los jueces y esto es una cuestión también

en síntesis cuál es la situación y sobre todo cuáles son las propuestas que hacemos nosotros de una forma constructiva insisto

y sobre todo siendo sinceros con todos en primer lugar hay que destacar la falta absoluta de transparencia en todo momento de todo este proceso ha habido un oscurantismo desde el inicio hasta la situación en la que estamos ahora y me temo que hasta el final ha habido una falta de colaboración con

y demás pero hombre eso no puede significar que se acabe

a las competencias que tiene esta cámara para ejercer su función de control y de fiscalización del gobierno falta muy importante un listado y un calendario de reformas

qué reformas pretende el gobierno hacer estamos por una parte

ahí tenemos un calendario legislativo hombre es verdad tenemos que realizar también un debate sereno serio y sobre todo analizando esas

no solamente porque hay que presentarlas junto con las propuestas de financiación sino también porque insisto esta es nuestra oportunidad probablemente la última para

falta también una comisión especializada y una agencia independiente que fiscalice el cumplimiento de los objetivos el cumplimiento de los objetivos los compromisos que se adopten y la ejecución de los proyectos hay que recordar y esto es muy importante hay que recordar y esto es muy importante que son proyectos para cuatro años

va a ser mucha cantidad de dinero para ser ejecutada en un periodo relativamente corto falta también aparte de todo esto yo creo que una clara voluntad de ser transparente el problema con ser transparente cuál es pues que le tienes que dar explicaciones y que luego

y de tus objetivos iniciales y esa es la forma en la que y es lógico que la oposición pida transparencia y bueno no es que sea entendibles el gobierno suele tender a ser lo menos transparente que puede pero hay que exigírsela y nosotros se la exigimos aquí en sede parlamentaria que sea lo más transparente posible en esta cuestión

es un proyecto de toda la sociedad y va a redundar en el beneficio

la reivindicación del proyecto europeo y la reivindicación del modelo europeo qué es el modelo europeo el modelo europeo sobre todo un modelo de gestión democrática con coordinación entre todas las administraciones estados miembros comunidades autónomas instituciones europeas

eso es el modelo europeo en segundo lugar también hay que destacar o nosotros destacamos que es muy importante reafirmar

en cada comunidad autónoma incluido también al gobierno central que siempre juega con ventaja por ver qué podemos sacar qué hay de lo mío qué tal

principal grupo que apoya al gobierno y luego el

y sobre todo que sean proyectos que se realicen no solo en coordinación con el gobierno central sino con otras comunidades autónomas de nuestro entorno

la rioja cantabria también navarra etcétera también nosotros

a esta cámara que se apruebe una resolución tendente a que el gobierno se comprometa a comparecer periódicamente y a ser posible cada mes

con datos con papeles para discutir cómo va la ejecución de estos proyectos y cuál es el estado de la situación y finalmente

pero sí un órgano especializado durante ocho años un poquito más de lo que va a durar la ejecución de estos proyectos para que fiscalice con independencia con autonomía con experiencia la ejecución de estos proyectos con la máxima transparencia esa es nuestra posición

una crisis más una simple crisis más sino que es una otra eso sí pero de las múltiples a las que

por los ciclos innatos al sistema capitalista esta crisis que viene desencadenada con una virulencia sin precedentes

sobre sus propias contradicciones hace ya demasiado tiempo

incierto enmarcado por las cada vez más frecuentes y agresivas por cierto crisis financieras y sus terribles consecuencias socioeconómicas

en marcha que pone en riesgo toda la vida sobre el planeta tierra y un sistema económico esquizofrénico

y la producción artificial de escasez mientras la reproducción de la vida el centro de la vida humana ha sido invisibilizado

la vida que ha sido sostenida sobre los cuerpos de millónes de mujeres que sin reconocimiento alguno en el hogar sufriendo la cara más precaria del mercado laboral nos han cuidado maría eugenia rodríguez palop gure lankidearen hitzetan

así pues en este contexto y que se haya constituido este fondo así como su espíritu transformador supone en sí mismo un logro más

porque es el reconocimiento a la dimensión histórica multifactorial y profunda de esta crisis

en la última década errores por cierto que

desde este gobierno se cometieron en un marco ideológico en el que siempre este gobierno vasco también se ha sentido cómodo es el liberalismo económico el dejar hacer el laisser faire pues bien el dejar hacer

a donde estamos las emergencias se superponen ya no es solo social

diez años antes del desmantelamiento de los servicios sociales la sanidad y la educación son muchos años nuestra sociedad es ahora más desigual y se encuentra gravemente fracturada a la unión europea tendríamos que pedirle más

pero a nosotros mismos como responsables como responsables políticos de la expresión popular en euskadi debemos autoexigirnos mucho más así nos lo exige el conjunto de la sociedad vasca también ezin dugu alferrik galdu

evidentemente ni en el contenido ni en las formas venimos también a este pleno a recordar que es nuestra obligación la de esta cámara el asegurar que nuestras competencias sean usadas para recuperar la ambición de la propuesta original del marco financiero

de la rebaja en el consejo europeo y eso puede hacerse diseñando los mecanismos necesarios para que los programas y los proyectos de la reconstrucción vayan de la mano con garantías de respeto

y a unos criterios climáticos ambiciosos para que vayan de la mano del compromiso de abordar de una vez por todas la creación de un modelo de cuidados también y de protección social de todas las personas que garanticen vidas que merezcan la alegría de ser

y esto pasa fundamentalmente por el refuerzo de los servicios públicos

de los derechos que nos aseguran en la sostenibilidad de nuestras vidas eta zerk jarri dezake arriskuan

gidatzea así que nos reiteramos en esta idea el sector público no solo crea riqueza sino que crea empleo de calidad

productiva investigación y desarrollo vínculos comunitarios y es el único ámbito que tiene capacidad de liderar la transformación estructural

social económico y sanitario que hemos vivido en este aciago año para caminar hacia una sociedad que sea más justa y

reconocemos la complejidad de ejecutar estas grandes partidas presupuestarias que hay que diseñar

en un horizonte temporal además que es muy limitado no es fácil y por eso mismo se deben crear los dispositivos públicos necesarios para capitalizar esta oportunidad

a la altura y lo que se nos plantea hasta ahora no es más que continuar

se sigue apostando por dejar toda la iniciativa al sector privado más bien al gran capital tantos años abandonados a las inercias neoliberales

de diseñar conjuntamente y de forma democrática un plan de país para el futuro el modelo

ha mostrado sus fisuras cuando nos ha golpeado el virus no podemos delegar la responsabilidad de la recuperación nuevamente

al capital extranjero esta fórmula ya la conocemos ya nos ha dejado una economía caótica y ecocida

deterioro de la calidad del empleo y una creciente desigualdad orduan esan genuen eta gaur ere berriro

podemos decir europa ha pisado el acelerador en la lucha contra el cambio climático y la transición energética en la apuesta de las energías renovables y el autoconsumo

seguimos con el freno de mano retrasando el fin de los combustibles fósiles invirtiendo dinero público en el gas evitando los impuestos al diesel

plantas de energía solar o eólica en manos del oligopolio energético en vez de fomentar el autoconsumo y la soberanía energética e incluso la construcción de nueva vivienda

y esto no tiene sentido esto es algo que debe acabarse en europa actualmente las nuevas viviendas y rehabilitaciones se orientan siempre a la electrificación total

del gas europa está acelerando su apuesta por la innovación y la digitalización francia y bélgica avanzan en el uso del internet las cosas o el big data para el control ambiental aquí en euskadi

mediante inspectores unos poquitos inspectores desprovistos totalmente además

in situ para cualquier labor de inspección falta de control y monitorización a tiempo real de los datos de los datos como pueden ser

tipología de residuos es decir lo que está ocurriendo realmente

es lo que determina luego causando graves incumplimientos

tampoco tenemos soluciones no se nos han dado soluciones en relación a las emisiones contaminantes de la incineradora de zubieta

o de erandio que ayer comparecían la ciudadanía de

o en último caso tampoco de la falta de control y trazabilidad sobre los residuos industriales peligrosos que se exportaban a libia para ahorrarse los costes del tratamiento

de control sobre lo que ocurre con las industrias contaminantes en euskadi es inaceptable

alde en otro orden de cosas existe el riesgo de que una vez más las recetas que pongamos en marcha para la reconstrucción social se piensen desde puntos de partida erróneos o

que no se entre las estructuras que están dificultando el día a día de todas las personas

decimos el día a día porque ciertamente muy pocas personas muy pocas personas habrán experimentado lo que es sentarse en las sillas de los consejos de administración de kutxabank por ejemplo

todas las personas aquí presentes hemos experimentado la enfermedad la dependencia o en algún momento de nuestras vidas la hemos experimentado o la vamos a experimentar y desde luego seguro todas las mujeres de esta cámara también tenemos también un relato vinculado

en esta materia digo por el hecho de ser mujeres pandemiaren hasieran bazirudien esaten zen pandemiak berdindu egiten gintuela inor

denak berdin jo hori da egia por eso nos preocupa también que a la hora de la verdad no hagamos apuestas transformadoras

sociales a los bienes comunes en definitiva a la construcción del cuarto de nuestro estado del bienestar en el centro del proceso de reconstrucción económico y social durante los próximos meses nos preocupa porque la mayoría de los debates que hemos tenido en esta cámara en lo que va de legislatura en torno a la situación de los servicios sociales en torno a la situación de la precariedad laboral que afecta a las mujeres trabajadoras del sector de los cuidados

al avance en las alianzas público privadas y la negación a abrir espacios de reflexión profunda

seguimos contando con la inercia de los cuidados que se proporcionan desde el ámbito privado y nos conformamos con parchear la crisis de la cadena global de los cuidados porque preferimos

la pobreza y la exclusión social preferimos gestionarla antes que anticiparnos a las encuestas que ya nos están hablando de ensanchamiento

incluso antes de la pandemia de esta manera somos una euskadi que cuenta con una ley de dependencia que por ejemplo reconoce que las personas sean preferentemente asistidas por un servicio

somos el territorio que más dinero reparte y menos servicios tiene dar dinero

en la práctica perpetuar los roles de género dar dinero por quienes son las que tradicionalmente han cuidado de las personas dependientes y hacerlo a costa además de precarizar los cuidados desde el gobierno central hemos conseguido al menos asegurar

hacia una economía de los cuidados en el listado inicial propio

lanzado por el gobierno vasco podrían señalarme uno solo que tuviera por objetivo el refuerzo del sistema de cuidados en euskadi no está

tenemos claro nosotras sí que en nuestro grupo tenemos claro que es un eje central que debería guiar el debate hoy en esta cámara y es dar

a los enfoques criminalizadores de la pobreza o que legitime la idea de que no cabe la protección para todas las personas porque la economía no da porque no dé para proteger a todo el mundo estos enfoques son injustos e inmorales en muchos aspectos nuestra apuesta es por el uso de estos fondos de inversiones que reviertan

aprovechando el miedo y la inseguridad que generan las pandemias como la que estamos viviendo porque eso eso sí que significa poner las vidas en el centro y la economía

demostremos demostremos que en este momento también que la transversalización de la igualdad de género que la inclusión del interés superior del menor y de la protección de la infancia

son motores de las principales inversiones que vamos a hacer en el futuro beste gai

de ahondar otros proyectos de menor envergadura quizás menos espectaculares pero con un impacto

en la reducción de las emisiones y en una mayor capacidad de creación de empleo

apuestas firmes por el transporte público y la mejora de los servicios de cuidados de la población dependiente la crisis industrial de las últimas cuatro décadas es un proceso inequívoco y solamente durante la última crisis la industria pasó de suponer el veintinueve por ciento del pib vasco a bajar a ser menos del veinte por ciento

los puestos de trabajo que se han destruido y los casos recientes de no gestión por parte del gobierno vasco demuestran que la inacción y la defensa patronal son

de reconversión industrial las ha dejado de lado en su lugar está apostando por un modelo de internacionalización

más a la americana cediendo todo el protagonismo al capital privado internacional que dicta la arena en la que jugamos y también equivoca lo que debemos hacer pero is not alternative hau da euskadiko ekoizpen

este último mes casualmente también a las puertas de la presentación del proyecto de presupuestos

en este parlamento pero no nos engañemos

parece que no quieren negociar nada sustantivo a la hora

se cierren todas las puertas y todas las ventanas y solo llaman digo yo a alguien llamarán a sus amigos

de las empresas que sean para ver cómo se reparten esos fondos

se jactan de practicar el gobierno abierto de transparencia participación colaboración pero en este caso la transparencia solo

al filtrar el listado de proyectos que habían elaborado ustedes solitos en los despachos y en este caso como en tantos otros la participación solo se da para las grandes empresas en este caso la colaboración

hoy aquí y ahora y para nosotros desde elkarrekin podemos ezker anitza tenemos los valores republicanos inscritos

en las instituciones democráticas por eso pese a la actitud del gobierno y los grupos que lo sostienen hemos trabajado en una

en las que se concretan los elementos que les acabo de exponer son sesenta y seis propuestas orientadas a dar solución a los problemas de la sociedad vasca en materia de empleo de vivienda de igualdad o de políticas sociales así como también para el refuerzo del sistema sanitario

entre otras de esta manera presentamos propuestas para una transformación del modelo de cuidados de euskadi

de digitalización de la enseñanza pública vasca que reduzca la brecha digital un plan para la continuidad de las empresas en crisis

y la apuesta también por el hidrógeno verde baina

porque los fondos de recuperación europeos son una gran oportunidad para la transformación de nuestra economía que va a poder avanzar hacia un modelo más sostenible

también para subirnos al tren de esta cuarta revolución industrial que todavía tenemos pendiente en euskadi

una profunda transformación social porque si lo hacemos bien

si pensamos en grande en la euskadi que queremos para las próximas décadas y no

vamos a poder impulsar reformas que van a suponer no solo un cambio en nuestro modelo económico sino también en la conciencia colectiva estamos hablando

hacia una economía de cuidados sólida y profesionalizada que se ha demostrado tan necesaria en este tiempo de atajar las desigualdades en el mercado laboral mirando especialmente a los jóvenes de impulsar un desarrollo urbano atendiendo a los colectivos más vulnerables del fortalecimiento de la educación pública de calidad no se trata de regar la economía con recursos millónarios como si fuera esto

el paso dado por europa para impulsar reformas que teníamos pendientes antes de esta crisis

en inaplazables este plan de inversiones nos va a permitir hacer esas transiciones que llevamos tiempo señalando que sabíamos que las teníamos que hacer pero que no

pues bien se acabaron las excusas este nuevo plan marshall como lo definió

pedro sánchez va a hacer de la actual situación de debilidad un motor de cambio

al calor de la construcción europea no podemos sino recordar el impacto de los fondos de cohesión europea fundamentales para el desarrollo económico de españa y también de euskadi

hoy como entonces europa se vuelve a poner en marcha con una movilización de recursos sin precedentes

aquella y por eso quiero que mi primera reflexión sea para destacar este nuevo hito para la construcción europea para esto queríamos unión europea para esto sirve precisamente europa

no la europa de la austeridad sino la europa del progreso equitativo de la igualdad y de la modernidad estos fondos marcan una diferencia sustancial respecto a cómo

se endeuda para financiar programas y no fondos por primera vez la unión europea hace un plan con deuda conjunta para afrontar inversiones

pero creo que no debemos perder la perspectiva de la importancia de este

y quiero destacar el importante papel que el gobierno de pedro sánchez ha tenido en todo ello porque el gobierno socialista ha estado en los últimos meses a la cabeza de las iniciativas lanzadas a nivel europeo para sacar adelante este proyecto que tras duras negociaciones

ese último escollo que era el veto de hungría y polonia finalmente va a hacerse realidad y lo hace

con un plan de recuperación transformación y resiliencia que según las estimaciones del gobierno va a impulsar un crecimiento económico por encima del dos por ciento de nuestro producto interior bruto

para el dos mil treinta que por cierto fueron la base de propuestas

y que inspiran también el programa del actual gobierno vasco un plan de resiliencia que nos habla

que habla de transición ecológica de cohesión territorial y social

un plan que pone encima de la mesa también la agenda feminista que de nuevo en esta crisis como ocurre en todas las crisis

las que sufren la mayor precariedad porque siguen siendo mayoritariamente las encargadas de los cuidados en el hogar porque el confinamiento ha sido especialmente duro para las víctimas de la violencia de género el plan del gobierno de españa pone el foco

en todas estas cuestiones y aprovecho para dejar una segunda reflexión

de qué estaríamos hablando hoy aquí si fuese el partido popular el encargado de negociar en bruselas y trasladar esos acuerdos a españa cuáles serían

de nuevo solo tenemos que hacer un poco de memoria para obtener la respuesta

federal eta parte hartzaileagatik la presencia socialista en el gobierno de españa ha sido fundamental para conseguir estos fondos pero también para decidir a dónde se dirigen porque aquí importa el qué

y el cómo es con perspectiva social de género ecológica y con voluntad transformadora el cómo es a través del cogobernanza porque las comunidades autónomas participarán

y serán agentes activos de los mismos más del cincuenta por ciento de los fondos van a ser ejecutados por las comunidades y esto da buena medida del espíritu descentralizado y colaborativo con el que el gobierno de españa

es también un desafío para euskadi porque como dijo el consejero de economía la semana pasada en la comisión esto va a exigir colaboración y transparencia mucha

y esto va a obligar indudablemente a que todos seamos serios debemos ser capaces de presentar un catálogo con proyectos realistas y viables

la renovación energética la modernización de la administración

pero sí quiero destacar que son áreas en las que los socialistas vascos venimos trabajando desde hace tiempo lo he dicho ya en las pasadas elecciones autonómicas hicimos el ejercicio de tratar de aterrizar esos objetivos de la onu para el dos mil treinta a nuestro suelo y a las políticas que podemos desarrollar en euskadi con nuestras competencias

en la que los socialistas venimos trabajando desde hace años en euskadi porque cuando hablamos de transición ecológica

por el aquí consejero iñaki arriola el que la pasada legislatura impulsó la declaración de emergencia climática con el objetivo de convertir a euskadi

y el proyecto de ley de cambio climático una ley integral con objetivos de reducción de emisiones y obligaciones tanto para empresas

con mecanismos para incentivar una baja intensidad energética y ayudar en la introducción de las renovables entre los agentes privados

respuestas contundentes para situar a euskadi a la vanguardia de la defensa del medioambiente pero sobre todo que han ayudado a consolidar

una conciencia medioambiental que es también la que inspira estos fondos y que se va a traducir ahora en proyectos y políticas concretas proyectos y políticas también

a los que se destinará el diecisiete por ciento de los fondos pensando

en las pequeñas y medianas empresas y quiero destacar la rápida respuesta del departamento de turismo comercio y consumo que en un momento muy delicado para el sector

y ha puesto en marcha en menos de una semana un programa de ayudas a la hostelería dotado con treinta millónes de euros ninguna otra comunidad autónoma ha actuado tan rápido y de manera tan contundente bien esa ha sido

pero tenemos que mirar más allá poner las luces largas y eso implica hablar de la digitalización del pequeño comercio

con las que no compiten en igualdad de condiciones y que ponen en riesgo su propia

ahí tenemos que estar las instituciones y ahí va a estar el gobierno vasco también y si hablamos de una nueva economía de cuidados y de consolidar el espacio socio sanitario

y ahí está como ejemplo la ley de servicios sociales del año dos mil ocho en la que los socialistas nos implicamos aprobándola desde la oposición primero y desarrollándola después desde el gobierno proyectos como etxean ondo el servicio de teleasistencia beti on

el decreto de cartera de prestaciones y servicios del año dos mil quince hemos avanzado mucho en la reflexión sobre el sistema

sin embargo todavía no hemos conseguido que a su alrededor emerja un sector económico estructurado y con empleos de calidad

porque otra enseñanza que nos ha dejado la covid es la cada vez mayor importancia del sector de cuidados el departamento de trabajo y empleo de la vicelehendakari idoia mendia está

por la profesionalización la consolidación económica y su vinculación con el desarrollo tecnológico y servicios y apoyo

en un mercado laboral de calidad y en un modelo de cuidados que posibilite una mayor calidad de atención a las personas mayores y a quienes requieren apoyos en su vida cotidiana y hay más porque no podemos hablar de regeneración urbana sin tener en cuenta la agenda

dos mil cincuenta impulsada también por el departamento de planificación territorial

porque hablar de urbanismo en el siglo veintiuno supone hablar de garantizar el acceso a viviendas de calidad de eficiencia energética de movilidad sostenible y de empleos de calidad porque cuando vemos que en euskadi los entornos urbanizados son el siete por ciento del territorio pero que acogen al setenta y cinco por ciento de la población

de la euskal hiria y a la hora de planificar esa gran ciudad vasca

a los retos ambientales sociales económicos y tecnológicos que nos vienen que ya están de hecho aquí y que eso se vea en el tipo de viviendas que construimos

en las innovaciones necesarias para hacer más viables cuestiones como el teletrabajo con esta idea el departamento de planificación territorial vivienda y transporte está trabajando ya en seis barrios laboratorio algunos ya concluidos como el de txomin enea en donosti y vendrán más en el futuro y podría seguir

cuyos primeros pasos ya dimos a través del plan de innovación pública la puesta en marcha de zuzenean y todos los avances en materia de transparencia y participación en el gobierno de patxi lópez

el fortalecimiento de la educación la cultura y también del deporte como instrumento de promoción de la salud la integración y la igualdad en nuestra sociedad

financiados con los fondos europeos raíles con clara voluntad transformadora y que ayuden a construir un futuro más sostenible e igualitario

la sostenibilidad la competitividad y el empleo este es el marco en el que nos movemos y sobre el que debemos trabajar

destacando la gran oportunidad que suponen estos fondos europeos especialmente para euskadi

por nuestra red de universidades y centros tecnológicos por nivel de bienestar somos una de las comunidades que mejor puede aprovechar la plataforma de transformación que suponen los fondos

probablemente solo madrid y cataluña puedan estar en nuestro nivel de conocimiento y competitividad y por distintos motivos ambas se encuentran sumidas en una gran inestabilidad política

es por tanto el gran momento de euskadi porque disponemos de la estabilidad institucional

y de la determinación para llevarlo a cabo con éxito es nuestra oportunidad pero lo debemos hacer entre todos juntos instituciones partidos empresas sindicatos universidades centros tecnológicos si algo se ajusta de proyecto del país tantas veces machacado es precisamente este

pongámonos ya a ello porque si hacemos esto bien si acertamos con los proyectos si no nos enredamos en disputas partidistas menores si empujamos todos

con empleos de calidad y socialmente cohesionada nos hemos cansado de repetir este año que esta crisis la tenemos que superar entre todos

es la oportunidad que tenemos todos y todas de demostrarlo tenemos todas las herramientas para dar un salto cualitativo europa fue capaz en julio de alumbrar

debe aprovechar el camino marcado y exprimir al máximo las posibilidades que nos ofrece ez dago beste biderik europak eskaintzen digun

gobiernos señor otero las elecciones fueron el doce de julio y gracias a nuestra apuesta por hacerlo porque llegamos a esperar a octubre y todavía hoy todavía estaríamos a por setas

también es curioso que en navarra habiendo cerrado también la hostelería en noviembre no haya habido ningún problema aquí

al respecto en la entrevista de la cadena ser el pasado veinticuatro de noviembre y digo literalmente lo que dijo

eso debe ser resarcido por parte de todos y todas porque es una medida social

la situación de los hospitales es una primera cuestión que debemos tener todos en cuenta kuriosoa

lo mismo con las escuelas en septiembre era una locura abrir el gobierno actuaba de nuevo desde la irresponsabilidad

alguna rectificación algún error que asumir todos cometemos errores pero hay que reconocerlos y corregirlos hay que digerir las contradicciones

y al día siguiente exigir la subida del impuesto al diesel que tanto afecta a ese sector de automoción y a sus empleos o decir que hay que subir los impuestos a las rentas altas y a renglón seguido defender la subida del impuesto al diesel que afecta a las rentas bajas y medias

saben ustedes que no es fácil gestionar la pandemia no ha sido fácil para nadie

todos nos hemos visto afectados y menos fácil será si prima la desunión en lugar del encuentro desde el partido nacionalista vasco hemos llamado una y otra vez a la responsabilidad política

y sería deseable por el bien de la sociedad que su actitud fuera otra pasar de la escenificación a la propuesta la colaboración y al acuerdo

por y para euskadi de quitarse complejos porque pactando con el pnv quien gana es euskadi

a mayores habéis mostrado una generosidad enorme en madrid

y eso sí lo aplaudimos y lo valoramos pero sería mejor jugar la partida primero en casa

entendemos desde eh bildu que es el momento de arrimar el hombro tenemos que ser constructivos en nuestras propuestas y sobre todo convencidos de que efectivamente en estos momentos de gran crisis de emergencia es cuando se pone

por tanto busquemos lo que nos une y trabajemos hoy con este debate tenemos una oportunidad y la tendremos también con la próxima negociación de los presupuestos pero me quedo en este debate el de los fondos para reconstruir euskadi

tenemos muchas interrogantes aún por despejar pero estoy segura de que todas y todos

aquí veremos que euskadi consiga el mayor volumen de recursos posible queremos que esos fondos

seguro que somos conscientes de que la gestión de este gran volumen de ayudas será complicada falta mucho trabajo mucho diálogo y muchos esfuerzos no dudo que ustedes lo vean así también pues todo esto

trabajo diálogo comunicación y dedicación igual no de la mano de eh bildu pero sí de la mano de los agentes sociales empresariales y económicos

y nadie ha hecho de esto un motivo de disputa sino más bien todo lo contrario se ha colaborado se ha contrastado y se ha contado con todos los implicados y se ha trabajado muy bien y se seguirá trabajando así desde el consenso y el diálogo no quieran trasladar a la sociedad una imagen que no corresponde con la realidad este gobierno

hacen falta muchas manos muchas ideas y muchísima coordinación

no puede invalidar todo un ejemplo de trabajo en equipo como está siendo este en cualquier caso saben

que el gobierno siempre tiene las puertas abiertas y que en cualquier momento pueden realizar sus aportaciones le recomiendo que además de las ruedas de prensa hagan llegar sus iniciativas al señor consejero han pedido este monográfico y lo estamos celebrando y está bien porque confío en que podamos terminar con un importante grado de consenso

creo que es lo que se espera de nosotros acuerdo para acelerar la salida de la crisis a través de estos fondos eso es lo que tiene en mente este gobierno

nuestros sectores estratégicos nuestras potencialidades y puntos débiles nuestras instituciones estén tranquilos porque no se va a escapar ningún proyecto susceptible de ayuda

complejo sí tiene sus fases y sus filtros no hay improvisación ni se va tarde señor otero vamos ajustándonos a la realidad del momento y de las fechas que se marcan desde bruselas o desde españa sin ir más lejos este domingo este era el titular de prensa este lo tengo aquí y os lo leo literalmente

europa desbloquea presupuestos y fondos tras varios meses de negociación y de elevada tensión con alguno de los estados miembros

para afrontar las consecuencias sanitarias económicas y sociales de la pandemia de la covid diecinueve

no solo a corto plazo sino a medio el consejo europeo celebrado los días diez y once de diciembre posibilita la aprobación del marco presupuestario plurianual de la unión y del plan para

y polonia el pasado domingo hace cuatro días quién ha ido tarde el gobierno vasco o la propia unión europea europa va tarde

beraz benetan usted cree que vamos tarde viendo esta noticia del pasado domingo doce de diciembre hay que renovar los mensajes y ser menos beligerantes

y lo cito la oposición anticipa una oposición beligerante del pleno del miércoles en el parlamento vasco

de la incertidumbre de la falta de participación de la poca participación con el resto de actores políticos

la crítica de poca participación del gobierno con el resto de actores políticos y sociales

este gobierno va todo lo rápido que puede y debe ir sin pausa pero sin prisa porque son trabajos que requieren madurez

sin caos ni codazos pero es que además como ya ha dicho antes no depende del gobierno vasco tenemos muchas limitaciones que vienen desde fuera y que nos condicionan

y hablar de cambiar del modelo de descentralización de los fondos en los distintos ministerios o de la creación de un único convenio con hacienda para poder gestionar desde aquí los fondos con nuestras competencias

hay muchos factores ajenos a este gobierno y que sin embargo marcan también su trabajo no se crean que son los únicos que quieren ir más rápido pero querer y poder en este caso no van de la mano como dice la frase el secreto para una vida exitosa es encontrar nuestro propósito y luego hacerlo beraz ekinbideari eta eskaerak ere europan eta madrilen ere egin

sus procesos participativos efectivos su preclara visión estratégica y sobre todo por su modelo de desarrollo humano sostenible la ironía no siempre se entiende bien en esta

el compromiso por el empleo y la reactivación económica ha sido reiterado

hacer lo que haga falta para mantener todo el empleo posible y recuperar todo el empleo perdido la estrategia está integrada en un proyecto global de país el desarrollo humano sostenible que contribuya al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible dos mil treinta de naciones unidas así mismo

que supone un marco de referencia global para alinear y orientar los recursos y esfuerzos públicos y privados hacia la construcción

a través del crecimiento sostenible e integrador que refuerce la cohesión social y territorial

estableciendo una relación de los ejes de su estrategia y los instrumentos europeos de recuperación de este modo el eje como antes decía el eje de reactivación económica

mientras que el eje de creación de empleo incluye las grandes dimensiones del programa react eu para la cohesión social y territorial este programa

estará compuesto por dos ejes y es fruto obviamente de un intenso análisis de las propuestas recibidas

en este eje estarán integrados los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica los perte vascos son estratégicos que persiguen posicionarnos y afianzar nuestra potencia en sectores de futuro que

sectores que permitirán mejorar el pib potencial de euskadi con intensa colaboración público privada en el ámbito de energías renovables

eta bigarren ardatza aceleración de ámbitos estratégicos a través de ocho competentes que son y digo que son a día de hoy porque ya les digo que el gobierno está en plena fase de contraste

bigarrena digitalización e innovación generación de energías renovables movilidad sostenible

hábitat natural prevención de desastres naturales eta azkenik salud y cuidado de las personas y me gustaría en este punto pararme en los cuidados zaintzan

se ha tratado aunque europa no lo incluye en los distintos marcos de referencia

el camino debe ir dirigido hacia propuestas transversales para transformar las políticas sociales con las personas mayores integrando proyectos que engloban el género el multisectorial

todo lo que sea para ser un referente en el envejecimiento saludable y activo nuestras nuevas competencias en los cuidados mejorando por ejemplo la calidad del empleo y transformando un sector muy feminizado

en resumen reformar y transformar el modelo de los cuidados sociales y sanitarios de la maduración de las personas mayores de dependencia y fragilidad y que el sistema de cuidados no solo recaiga

pertsonak erdigunean izanda y esto no debe sorprender a nadie porque está alineado con nuestras directrices presupuestarias y no de este año sino también de al menos

uste dugu eta alineado con nuestros retos y con el despliegue de nuestras políticas públicas nuestro programa de gobierno y nuestra estrategia de especialización inteligente reconocida por la unión europea con este plan se va a construir también se va a contribuir también a consolidar y fortalecer el autogobierno vasco impulsando la presencia vasca y su proyección internacional

hori hobeto bideratzeko bruselas no solo nosotros

porque están más cerca conocen mejor el aparato productivo tienen dinámicas estables y fructíferas de cooperación y competencias y dinámicas para gestionar estos fondos de manera eficiente

esta aportación regional por lo que desde el partido nacionalista vasco esperemos que los estados como antes traía aquí el señor otero mis palabras que los estados superen la tentación de gestionar estos fondos de manera centralizada y en solitario

una mejor gestión de nuestras competencias y respetando nuestro ámbito competencial hay temor parece ser de hablar de la europa federal pero cuanto más crisis más europa pide la ciudadanía y así se refleja en las últimas encuestas

posible de la ciudadanía y aquí me gustaría citar

quien merece un puesto destacado en esta relación posiblemente el más intuitivo de futuro y en mil novecientos cincuenta y seis escribió un mensaje a la juventud vasca bajo el título la causa del pueblo vasco un libro de vigorosa actualidad y que todo y toda joven vasco debería leer

séptimo titulado desde la nación vasca a europa y al mundo hoy solo se hace la europa de los estados la que era más fácil de hacer porque hay prisa en hacerla porque uno de los acicates en la organización europea es el miedo

y en esa europa nadie podrá negar un puesto a nuestro pueblo a ese pueblo federalista y pacifista cuando la noción actual del estado sea rebasada cuando europa se asiente sobre las bases más naturales más justas y menos hipócritas

si lo quieren los jóvenes el concierto de las naciones europeas podrá ser una realidad que prepare la federación universal por tanto una vez más reiteramos nuestra vocación europea

y participar en estos momentos claves también el pueblo vasco beraz laguntzak emateko modua europaren egituraketaren isla ere bada estatuen europaren isla da

hablamos de una cantidad de dinero sin precedentes que sin duda exigirá un esfuerzo de coordinación y colaboración importante entre las distintas administraciones y con europa reclamamos

porque lo que hagamos hoy determinará nuestro futuro debemos estar al pie del cañón peleando por nuestro hueco y euskadi tiene una ventaja

y en sectores tractores tiene un modelo de colaboración público privada que está funcionando industria por la que señora gorrotxategi le recuerdo apostamos nosotros cuando el segundo sector era sucio y nadie quería apostar por ello

gracias a esa apuesta nuestra apuesta y porque sabemos qué país queremos tenemos esta industria avanzada que se reinventó porque otro dogma económico del que hemos escapado señora gorrotxategi es la apuesta exclusiva por el sector de servicios dejando al lado

una apuesta equivocada que aplicaron por ejemplo en el reino unido y que hoy tratan de revertir con muchos esfuerzo y dificultades nosotros sabemos qué país queremos

el panel europeo de indicadores de innovación clasifica a los países según la capacidad de innovación en cuatro grupos

países con alta innovación países con innovación moderada o países con baja innovación ya os lo han dicho en ocasiones anteriores diferentes sailburus y como explicación más reciente el sailburu

que como tan claro quedó me gustaría traer hoy esas cifras para ver cómo

nos pone una mejor posición de salida para la recuperación aunque en esta tribuna se han mostrado

euskadi ha consolidado la posición entre los países europeos con alta innovación

en concreto representa el noventa y nueve coma uno en el año dos mil diecinueve cuando en el año dos mil doce

y alcanza los mil cuatrocientos ochenta y uno millónes de euros es decir el uno coma ochenta y seis por ciento sobre el producto interior bruto en dos mil diecinueve

el uno coma veinticuatro la cifra de euskadi supone cincuenta y ocho millónes de euros más que el año anterior es decir un cuatro coma uno por ciento de incremento afianzando por cuarto año por tanto consecutivo una etapa de crecimiento en el gasto

de gasto desde un punto de vista de empleo supone casi

si nos centramos en el personal investigador aumentó más que la media en concreto un dos coma siete por ciento hasta los trece mil quinientos veinte la apuesta estratégica

un seis coma tres por ciento más que el año anterior y este es nuestro compromiso

tanto el sailburu bildarratz como el sailburu azpiazu el aumento de un seis por ciento en esta legislatura

que son buenos ingredientes para que nuestras instituciones nuestro gobierno

y para transformar nuestra economía euskadi tiene trayectoria reconocimiento y un sector productivo que está trabajando en proyectos de futuro desde la automoción a la aeronáutica energías máquina herramienta sector naval transporte más allá del covic nuestros sectores e instituciones se están moviendo y euskadi

proyectos solventes para aplicar estos fondos europeos a la recuperación y modernización de la economía los estados miembros

somos el piloto de esa recuperación pegada a la territorialidad y en este punto nuestros ayuntamientos

si los proyectos municipales son viables factibles y medibles pues serán proyectos que optarán obviamente a los fondos con lo que limitarles los recursos no tendría mucho sentido

y con eudel en reuniones técnicas pero es importante que las entidades municipales se beneficien de los fondos europeos pero debemos también ser conscientes de la enorme dificultad de la inmensa mayoría de los ayuntamientos vascos

para europa sería ingobernable gestionarlo todo con los doscientos cincuenta y cinco ayuntamientos en tan poco tiempo para ello planteamos debates sobre políticas sociales por cierto ya que eh bildu lo ha utilizado en más

eh bildu dice que europa siempre ha animado a abrir un debate amplio y con diferentes fuerzas políticas y no es así la traducción literal

dice abrir un debate amplio sobre políticas públicas no con fuerzas políticas

y que por tanto espero que con este matiz se zanje el tema porque sobre políticas públicas sí hay un debate

en relación con el acuerdo estoy hablando de los temas municipales y en relación con el acuerdo del veinte de mayo suscrito por eh bildu con el gobierno de españa

acuerdo que tengo aquí en el segundo punto se acuerda

me gustaría saber si a ese respecto habéis logrado algo era según vosotros un acuerdo magnífico

y así lo habéis salido a defender en numerosas ocasiones tengo aquí un montón de artículos en el que salís a defender este acuerdo pero

y que ibais a por derechos sociales para euskadi jakin nahiko nuke

ezer ere ez y no os olvidéis que gracias a nuestro acuerdo sí al nuestro

los municipios tendrán capacidad de endeudamiento a través de las diputaciones forales porque ya sabéis que la tutela financiera de los municipios recae en las diputaciones por tanto

y si además pueden gastar el superávit que por cierto hay mucho y si no

ya hay una manera y lo hemos peleado nosotros por lo que os vuelvo a decir os agradecería que trajerais esta tarde propuestas con viabilidad política y factibilidad técnica nosotros creemos que la comisión interdepartamental encargada de desarrollar euskadi

que pueda atender proyectos y actuaciones en el ámbito municipal a través de líneas subvencionables que impacten en los componentes recogidos en dicho programa por ejemplo relacionados con el hábitat natural y urbano movilidad sostenible y eficiencia energética

por tanto detectar ámbitos en los que nuestros ayuntamientos puedan entrar y así los fondos se puedan capitalizar será nuestro objetivo y así lo propondremos esta tarde solo me cabe ya para finalizar expresar mi deseo de que entre todos los grupos tratemos a través de nuestras resoluciones de ayudar al gobierno

pero que por supuesto puedan ser mejoradas pero no podemos obviar el camino ya recorrido confío en que esta tarde podamos aprobar unas buenas iniciativas que refuercen

porque todos y todas queremos lo mejor el mejor proyecto el mayor volumen de ayudas a este respecto me gustaría comentarle un par de cosas

y es lo que acaba de decir esta mañana que los fondos europeos van a marcar nuestro futuro

yo creo que nuestro futuro lo tenemos que marcar nosotros y es lo que tenemos claro los fondos europeos refuerzan la inversión en sectores clave ya identificados por el gobierno en las instituciones

no nos marcaron a nosotros el futuro al señor gordillo ha mencionado usted la extrema politización del proceso de europa next generation

porque han de ser los representantes de la ciudadanía los que deben gestionar los recursos públicos desde nuestro grupo por tanto no estigmatizamos el factor político del proceso si bien entendemos que los criterios a la hora de otorgar las ayudas han de ser el realismo y la viabilidad empresarial de los proyectos destinatarios de las ayudas claro que queremos que sean ayudas multiplicadoras

creando crecimiento empresarial y empleo de calidad de igual forma la forma de evaluar el desempeño de las ayudas ha de ser esencialmente pública

o de cualquier otro ramo la instancia en los centros de decisión es en ocasiones un activo de la política contar con la unión europea para este proceso de evaluación será sin duda un acto

pues le digo sinceramente que apreciamos su posicionamiento en favor de un estado descentralizado

gorrotxategi andreari gauza pare bat hay una cosa que me alegra de su intervención me alegra que comparta el enfoque del gobierno de que la inversión pública es el motor de la recuperación beraz badugu elkarrizketarako bide bat

hagamos todas y todos un esfuerzo acompañemos al ejecutivo en esta labor eta beste

egun on sailburuok legebiltzarkideok ciertamente resulta curiosa para el gobierno la manera en que se ve incorporado a este pleno monográfico

para dar cuenta de los pasos dados en la definición del programa de recuperación y resiliencia de euskadi conocido como

y aunque soy consciente de la distinta dimensión que tiene este debate más de orientación estratégica y menos de gestión

el órgano legislativo y las funciones del ejecutivo por ello este gobierno confía en que en sentido positivo

la manera de hacer próxima en esta materia así como también los sucesivos pasos a dar en la forma de orientaciones estratégicas y a ellas

en la que por otro lado los diferentes grupos parlamentarios también tuvieron

aukera no voy a extenderme por tanto más de lo necesario porque todas y todos ustedes cuentan con la información de la que dispone el gobierno en este momento

para el desarrollo de este debate por ello quiero recordar

es aportar inversión pública y privada a escala europea con objeto de lograr una recuperación sostenible y resiliente

y reparando los daños inmediatos causados por la pandemia al tiempo que respalda las prioridades ecológicas y digitales de europa next generation

acometer reformas e inversiones que promuevan la cohesión

de la unión aumentando la resiliencia el potencial de crecimiento

mitigando el impacto social y económico de la crisis y apoyando la transición ecológica para conseguir el objetivo de la unión europea de neutralidad climática

económica y social y a la creación de empleo como dije la pasada semana la orientación estratégica del mecanismo de resiliencia y recuperación está muy vinculada

confirmando el objetivo de la unión europea de perseguir una nueva estrategia de crecimiento basada en el pacto verde

de sostenibilidad competitiva entendiendo en sus cuatro dimensiones

la productividad la equidad y la estabilidad macroeconómica todas estas variables sin prejuicio de las que pueda determinar la normativa europea que ponga en marcha

así como las condiciones y requisitos que pueda establecer el estado español condicionarán por tanto la orientación estratégica del destino de dichos fondos europa ha tasado de forma clara los ámbitos de acción aldagai horiek

no digo yo que no le quede espacio a este parlamento para desarrollar esas orientaciones

lo contrario sería navegar en el vacío según la información de la que disponemos españa pretende enviar una primera versión de su plan

por lo que euskadi debería enviar a su vez su primera versión este mes

veintinueve de diciembre el consejo de gobierno aprobará

en el suyo propio una vez españa envíe su plan que constituirá

serán las instituciones europeas las que determinen si los proyectos y actuaciones incluidas en el mismo

unas propuestas que han de responder a las exigencias europeas

y de los hitos marcados en nuestro programa condicionará la recepción de los fondos por tanto es necesario un escrupuloso rigor al seleccionar los proyectos ya que deben estar ejecutados como saben para el treinta y uno de agosto del año dos mil veintiséis

importancia realizar un planteamiento realista y viable como les decía el pasado miércoles un programa propio con un planteamiento estratégico de país que permita que nuestras propuestas tengan cabida en el plan que debería enviarse a europa

cuya orientación deberá contribuir a los ámbitos emblemáticos identificados por la comisión la puesta en marcha de tecnologías limpias la aceleración del desarrollo

acelerar el uso de un transporte sostenible accesible e inteligente el despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida a todas las regiones y hogares

el aumento de las capacidades industriales en materia de datos en la nube y el desarrollo de procesadores de última generación y sostenibles y la adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales

profesional en todas las edades no olvidemos que el gobierno cuenta con su presupuesto ordinario es decir

no quiere decir que no se vaya a hacer si no que se tendrá que hacer con los recursos propios

quiero advertir de las expectativas y malos entendidos que considero que ciertos mensajes

los fondos europeos son muy importantes y vamos a realizar un trabajo impecable para

pero no son la única fuente de ingresos con la que cuentan las instituciones vascas

nuestro propio marco de referencia que no es otro que el programa de gobierno dos mil veinte dos mil veinticuatro euskadi en marcha y el programa berpiztu

a la altura de nuestro país el gobierno se encuentra en fase de contraste con las instituciones vascas y con los agentes económicos y sociales para seleccionar proyectos que se ajusten a las directrices europeas y sean auténticos motores de reactivación económica generación de empleo y de transformación de nuestros sistemas productivos como ya les

se articulará en torno a dos ejes un primer eje

y transformación económica vascos con una importante colaboración público privada y público pública

la inteligencia artificial la ciberseguridad el transporte sostenible

y un segundo eje atendiendo a la aceleración de las inversiones en determinados ámbitos estratégicos tales como la salud y el cuidado de las personas

la digitalización e innovación la generación de energías renovables la movilidad sostenible

de desastres naturales respecto a la absorción por parte de las entidades locales el gobierno vasco lo que está planteando para poder dar más relevancia al ámbito municipal que la que se ha plasmado en los presupuestos generales del estado que incluyen mil doscientos treinta y tres millónes

incluyendo grandes capitales y municipios pequeños y para respetar nuestro sistema de financiación diferenciado es poder hacer que algunos de los componentes

tengan la suficiente capilaridad como para llegar a proyectos municipales

eficiencia energética movilidad sostenible etcétera es necesaria una visión de país se debe trascender a qué institución llegan los recursos y dar paso a qué inversiones conseguimos

ser capaces de absorber la mayor cantidad de fondos con el planteamiento más pragmático y realista posible el cien por ciento de lo que llegue a euskadi

en nuestros pueblos y ciudades no quiero obviar que como también les dije existen muchas incertidumbres respecto a la fórmula de acceso a los recursos europeos

lo que hemos priorizado desde el gobierno vasco es poder contar con un programa estratégico propio que respete y encaje en las directrices europeas aunque luego deberemos ser flexibles

que pueda establecer el gobierno español con el fin de poder acceder a la mayor cantidad de los recursos posible se nos ha asegurado que las comunidades autónomas participarán en la gestión de los fondos

por diversas vías aunque todavía no se han concretado

las consignaciones presupuestarias en los diferentes ministerios que

estos fondos extraordinarios y adicionales incrementarán el presupuesto ordinario que esta cámara eventualmente apruebe para el ejercicio veintiuno y años sucesivos pero como ya hemos reiterado debemos ser muy cautelosos dado que aún falta concreción jurídica

de estos mecanismos extraordinarios de financiación así como una más concreta especificación por el gobierno del estado de los requisitos y condiciones para la gestión de los mismos

para el año que viene aprobado ayer mismo en el gobierno

sin embargo como podrán comprobar mañana mismo tras su calificación por la mesa del parlamento

se incluye un conjunto de disposiciones con el fin de facilitar la incorporación de dichos fondos a los presupuestos generales de euskadi y su ejecución presupuestaria así como la tramitación administrativa de las actuaciones y proyectos que financien dichos fondos me gustaría terminar invitando a los grupos de la cámara a pasar de este momento de escenificación a uno de materialización de acuerdos

general de euskadi para el año que viene tengan por seguro que nuestra intención como gobierno es trabajar lo mejor que sabemos para conseguir un programa ambicioso que sea capaz de traer

creo que este es el objetivo de todos los presentes para definirlo contamos con la confianza de una mayoría de la ciudadanía vasca y tengan por seguro que nuestra forma de proceder seguirá marcada por contrastar con agentes económicos y sociales y con otras instituciones con transparencia sí

eskerrik asko gracias señor azpiazu se va a proceder ahora al turno de

tiene la palabra el grupo proponente el

clave que ya se están llevando a cabo y que aquí vamos a salir con nuestros fondos y precisamente estos fondos van de disrupciones

las cosas de otra manera y usted y es verdad o sea así lo entienden

sacar todo lo que tenían por ahí y ponerlo a ver si colaba no eso es reforzar las inversiones que ya se estaban realizando y no hacer una reflexión de por qué

a hablar pararse a diseñar y a partir de ahí hacer un proceso disruptivo que cambia la situación en la que estamos por lo tanto creo que no han entendido nada eta

hitz egin du que se ha colaborado se ha consensuado se ha dialogado se ha trabajado con equipo

que vamos aviados en medio año no hemos tenido posibilidad de contrastar nada beraz iruditzen zaiguna da hemen

horiek ontzat eman direla y que a partir de ahí se está huyendo hacia delante se está pidiendo al gobierno por parte de los grupos que los sujetan que sigan que culminen este proceso este proceso que para nosotros es incomprensible yo diría que no solo para nosotros porque si vemos el documento que hizo

acerca de la segunda lista que ya incluía algunos proyectos de diputaciones y ayuntamientos y ustedes me dirán que esta ya

dejaba en evidencia cómo había varios de los problemas de lo que estoy hablando aquí se insistía

y se les decía esto no es lo que se está buscando desde europa y hay otro problema que es el tema

que había proyectos de gobierno de una diputación de un grupo de empresas hasta el punto que

a ver si esto lo pueden ordenar un poquito porque hay un montón de proyectos que tienen que pueden ir hacia los mismos cajones o hacia los mismos sitios

el centro de fabricación avanzada el centro de excelencia mundial de vehículo eléctrico el desarrollo de la seguridad de vehículo autónomo lo que nos está dando una pista una pista de lo que estaba diciendo yo en la primera intervención

un ejercicio imposible o aparentemente imposible de equilibrio entre clientes preferentes habituales a los que

en vez de hacer un proceso al revés en el que primero se diseña digamos la clasificación de lo que queremos mandar y a partir de ahí se pone

y de hecho es curioso porque nosotros les estamos diciendo que ya hemos hecho nuestro propio trabajo y que

cuando tengan a bien en abrir esa lata de la que hablamos y resulta que por detrás nos están viniendo

personas de diferentes departamentos del gobierno preguntándonos

en un proceso completamente caótico por eso digo que el proyecto era completamente caótico denbora oso gutxi dago gauza asko dago esateko

larritasun bat mucho nerviosismo en la bancada del pnv a tenor de la intervención no se preocupen esto no es ninguna asalto ningún asalto no estamos tirando las escaleras para subir por las murallas

les preocupa mucho no que nos estaban preguntando a ver si somos actores importantes en madrid

que para qué queremos los fondos pues evidentemente lo que queremos es

hacer un diseño de cuál es el futuro que pensamos para este país

década y a poder ser hacerlo de una manera consensuada porque insistimos porque insistimos y es verdad que veo que les preocupa el tema nosotros estamos insistiendo en la idea de que esto supera al gobierno esto se va a ejecutar hasta el dos mil veintiséis va más allá de la legislatura

y aquí mal que les pese no van a estar siempre ustedes en el poder no pasa nada no pasa nada por intentar hacer un ejercicio

de acuerdos mínimos para ver lo que podamos defender todos en madrid sí porque todos vamos a tener algo que decir en madrid y no estoy hablando de euskal herria bildu

del resto porque entiendo que si es un proyecto un programa consensuado pues tendríamos un poco más de posibilidades lo dejo aquí no tengo más tiempo

gracias señor otero

euros por parte del gobierno que más que en fondos de reconversión lo han convertido en bote para pagar las rondas de la cuadrilla el ejecutivo que

afectadas sean del tamaño que sean también a los autónomos y a todo tipo de personas así como a los sectores que sufren mayores apuros

no pasan ahora mismo por especiales apuros en euskadi como para invertir grandes cantidades de estos fondos en ellas todo esto que ha apuntado

por el que se apuesta en nuestra región el modelo económico que persigue el pnv secundado por su socio pse apuestan por un país vasco

es eso lo que de verdad pretenden porque el agujero que van a provocar es de enorme tamaño el que se deriva de dejar en el olvido a aquel sector que tan mal lo está pasando

la mitad del pib de nuestra comunidad autónoma y siendo esta la evidencia qué interés hay detrás de un reparto así de estas ayudas y de estos fondos

tal vez el interés de contentar a los propios en detrimento del interés general de todo

el futuro cercano con un auténtico terror al futuro también más lejano estamos hablando de miles de empresarios al borde de la ruina

estamos hablando de miles de trabajadores que ven peligrar su empleo si no lo han perdido ya estamos hablando de miles de familias que dependen de un modelo de negocio que ustedes

al olvido les han utilizado como chivos expiatorios mientras permitían a otros sectores actuar con absoluta irresponsabilidad cuando no

como viene siendo habitual y a modo de conclusión quiero poner el acento en algo a lo que este gobierno y el principal de los partidos que lo conforman nos tienen ya acostumbrados

esa obsesión en atender las necesidades de las administraciones públicas y de los partidos que las dirigen dejando de lado el modelo económico de toda la región de una vez por todas

debería servir a los intereses del país y no solo a los de un partido y sus afiliados tiene el deber de administrar la comunidad en lugar de dedicarse a la propia administración para sacar adelante sus gastos e intereses públicos

ustedes reclamaron de sánchez máxima transparencia en la gestión de los fondos que van a llegar de europa y me pregunto si ustedes no están obligados a esa misma transparencia en el diseño de proyectos en la gestión de los fondos que lleguen al país vasco yo creo que en este punto todos coincidimos ustedes

ustedes están obligados a propiciar la máxima participación posible ustedes han de primar las ayudas para los sectores más castigados por la crisis

de justicia es su responsabilidad solo esperamos que el reparto de estos fondos no acabe como el caso hiriko caso que el gobierno conoce además muy en profundidad
muchas gracias gracias señora martínez

tiene la palabra el grupo popular ciudadanos señor gordillo

bueno pues en el debate que hemos tenido la verdad es que casi más que debate lo que estamos teniendo es un pues una sucesión

cuál es la situación relativa a estos fondos pero yo lo que no veo es un debate de profundidad y asumo también mi culpa a mí me gustaría aquí debatiéramos en concreto pues que

a trabajar por que estos dineros europeos esta financiación pues nos lleve realmente a realizar una serie de medidas y de proyectos ambiciosos que cambien la economía

por hacer un brevísimo repaso pues el grupo proponente pues ha hecho mucho hincapié en que tienen que participar los ayuntamientos claro que es donde ellos tienen poder territorial los otros le dicen no no ya participa el gobierno vasco y las diputaciones que es donde los otros no tienen poder territorial no en el fondo esto es un poco una pelea quítate tú que ya me pongo yo el grupo pues de elkarrekin podemos

de utilizar estos fondos para hacer su propio programa político bueno es curioso que entre eh bildu y elkarrekin podemos se da

de en el fondo para eh bildu todos los problemas que tiene la sociedad vasca se derivan de que somos una nación y carecemos de estado cuando seamos un estado todos los problemas van a desaparecer automáticamente en el caso de podemos es todos los problemas derivan de que no somos una sociedad pues no sé si denominarla marxista o absolutamente

y en el caso del grupo principal que apoya al gobierno del pnv

y ya está no hombre con los fondos europeos yo creo

no hemos entendido nada si creemos que esto va a ser pues simplemente una repetición de los fondos de cohesión los fondos feder

aquí lo que hay que hacer es plantear una serie de proyectos que sean competitivos bien pensados bien estudiados y con un fondo

tanto el grupo proponente como no sé si elkarrekin podemos igual me equivoco

en el que se condicionaba la transferencia de fondos y demás a que hubiera una liberalización de la economía además una liberalización bastante potente que por cierto es lo que hizo que luego pues se recuperara la economía no a base de la liberalización de la economía digo si quieren poner un ejemplo pues está bien que pongan el plan marshall yo la verdad es que eso lo secundo

hay que seleccionar los proyectos de acuerdo con criterios objetivos

esto es el cambio de cromos de siempre es el cambio de cromos de siempre no no se preocupe que va a ser

el señor azpiazu en la comisión de economía y presupuestos el presupuesto va a ser maravilloso no van a tener más remedio que apoyarlo no es

pero hombre yo que sé es decir yo creo que aquí lo que hay que hacer es establecer bien cuáles son los criterios y ya está no oiga mándeme las propuestas nosotros estamos abiertos a recibir propuestas y sugerencias hombre

pero es que de eso se trata este debate también para poder mandar propuestas siempre hace falta saber con qué condiciones una convocatoria una metodología de selección cuáles van a ser los criterios de evaluación

que es con lo que nos hemos quedado la verdad ganas pero más que propuestas en concreto sobre todo lo preocupante aquí es el proceso se van a llevar una sorpresa y no es descartable que muchos de los proyectos que entren no sean finalmente subvencionados porque insisto aquí va a haber una evaluación por parte de las instituciones europeas esto no europa no esto no van a ser los fondos feder y europa no va a permitir que esto sea una repetición del plan e de zapatero

en serio que las propuestas que hacemos desde nuestro grupo que vamos a hacer y que las circularemos entre el resto de grupos también van un poco en esa línea son propuestas

y a favor de una transparencia y un uso racional y coherente de estos fondos

insisto otra vez a costa de una deuda que tendrá que pagar la generación futura en primer lugar por sintetizar y ya con esto termino mi intervención en primer lugar de lo que se trata es de que reconozcamos sobre todo y es muy importante esto de que reconozcamos el proyecto europeo europa se encuentra también en un momento de crisis y es importante que desde las instituciones públicas reivindiquemos la importancia del proyecto europeo aquí hay partidos que luego en europa se sientan del lado de grupos que ciertamente no son de los más europeístas

se posicione a favor del proyecto de integración europea como un proyecto además que sí que es un proyecto de colaboración es un proyecto de coordinación es un proyecto de progreso es un proyecto de futuro

con datos con papeles con objetivos concretos también es importante yo creo que es muy importante que se haga público cuanto antes la metodología

se van a seleccionar los proyectos que van a competir

como qué metodología se ha empleado y haciendo pública toda la documentación que ha manejado esa comisión interinstitucional

que se desarrollen protocolos de colaboración con el gobierno central y con los gobiernos del resto de comunidades autónomas para establecer o para llevar a cabo una mejor ejecución

con este dinero con estos fondos también es muy importante que seamos consecuentes tenemos la oportunidad antes lo decía me parece que lo decía muy bien el señor andueza el portavoz del pse es una oportunidad que tenemos ahora y hay que ser ambiciosos en este sentido pues mire yo le tomo la palabra

necesitamos de acuerdo con las conclusiones y con las propuestas del semestre europeo también es importante que exista un control del gobierno en lo que va a ser la ejecución el gobierno tendrá que designar una autoridad que puede ser el departamento de economía podrá ser otra autoridad

de hacer también un seguimiento por parte del ejecutivo de la ejecución de los proyectos pero sobre todo que sirva de enlace con el gobierno central a efectos de la coordinación pues bien aquí es muy importante también que se dé cuenta periódicamente a este parlamento

los distintos grupos si no venir con datos con información con papeles para llevar a cabo un análisis serio de cómo va la cuestión y finalmente yo creo que es muy importante también mandar un mensaje claro tanto a la ciudadanía como a las propias instituciones europeas de que todo este proceso

que se hiciera a nivel nacional en españa que se establezca una autoridad

pero un organismo que sea realmente autónomo independiente

de fiscalizar la ejecución de estos proyectos y que este organismo comparezca también periódicamente preferentemente cada trimestre ante este parlamento para dar cuenta de cómo va la ejecución de estos proyectos que insisto no son los proyectos de este gobierno del grupo

pp ciudadanos de ninguno estos proyectos son los proyectos de la siguiente generación

tiene la palabra el grupo elkarrekin podemos

egin behar zela horixe entablar lo antes posible un amplio

que integre a todas las partes interesadas pertinentes en la preparación de sus planes de recuperación y resiliencia lo antes posible amplio diálogo político todas las partes interesadas en la preparación de planes de recuperación hori nola itzultzen da hona etortzen baldin bagara nola itzuli da

seguimos siempre venimos con la esperanza de que el gobierno haga gala de lo que tanto se jacta y tan poco practica que deje de lado el rodillo y que la puerta al diálogo y a la colaboración genuina básicamente lo que les venimos a pedir es que abran las puertas

y que escuchen de una vez por todas al conjunto de toda la sociedad vasca no solo a algunos de sus amigos

la sociedad vasca eskerrik asko gracias señora
gorrotxategi tiene la palabra el grupo socialista

eskerrik asko mahaiburu jauna bueno yo creo que si ha habido un elemento común entre todos los partidos de la oposición es que la acusación ha sido constante al gobierno de no dar oportunidad a que los diferentes grupos de la oposición participen se ha acusado al gobierno de que decide

y presentar propuestas yo creo que el ejercicio que estamos haciendo hoy es un perfecto ejemplo de debate de trabajo conjunto una oportunidad precisamente a los grupos de la oposición para que presenten sus propuestas las podamos conocer y las podamos debatir y creo que hoy por la mañana se ha generado un debate bastante precipitado

equivocado escuchando algunos planteamientos de algunos grupos de la

es injusto que se hable de falta de participación de falta de conocimiento de los grupos de la cámara de los proyectos que van a formar parte del programa euskadi

este pleno monográfico como decía es buena prueba de ello esto está siendo un ejercicio

cuando menos en la sesión matutina de saber cada cual qué objetivos tiene y por dónde van a ir las propuestas que

miren el veintinueve de diciembre el consejo de gobierno aprobará una primera versión del programa repito una primera versión del programa a partir de ahí el gobierno de españa tiene hasta el treinta de abril para

haga las apreciaciones oportunas con lo cual repito estamos hablando de una primera es decir queda recorrido se empieza un proceso que indudablemente

y que vamos a tener tiempo más que de sobra para discutir para analizar y para hacer propuestas es decir la mayoría de las transferencias no reembolsables del mecanismo de recuperación y resiliencia que es

tienen que ser comprometidos por la comisión europea entre el año veintiuno y el veintitrés

con lo cual díganme ustedes si no tenemos tiempo todavía para debatir sobre esta cuestión

europeo siguen afinando los criterios que deben cumplir cada uno

sigue habiendo tiempo y este camino no ha hecho más que empezar y como ocurrió con los fondos

no es algo de un momento concreto es algo que se va a prolongar en el tiempo y que va a marcar muy probablemente la agenda política de los próximos

ya se están haciendo de hecho como las líneas ico es decir esto no va

a inventarse ahora sino que incluso hay cosas que ya se están haciendo no va de ponerse a buscar proyectos debajo de las piedras porque incluso hay muchos proyectos que ya tienen su base asentada que ya están desarrollados es decir que tienen una base sólida sobre la cual podremos

hablamos de líneas ejecutadas que se van a reembolsar en un periodo

de oportunidades es muy amplia no estamos hablando de algo cerrado de algo concreto de algo que tenga que decidirse

que lo he dicho en mi intervención inicial los fondos europeos creo que se van a proporcionar se van a disponer en función de la credibilidad de los planes

de los grupos de la oposición esto nos va a obligar a todos absolutamente a todos a ser serios y a presentar proyectos que sean realistas que sean viables y que efectivamente se ciñan a las necesidades que realmente tenemos y al objeto que ha hecho

de involucrarse en esta situación y de destinar esa nada desdeñable cantidad de millónes de euros

salir fortalecidos de esta crisis por tanto creo que tenemos la responsabilidad todos y todas de trabajar las cosas bien y de trabajarlas con rigor se hablaba

es una buena metodología lo cual no quiere decir que se esté dejando de lado la participación de los grupos políticos y de otros colectivos y de otras entidades para nada

es una buena base y ese propio diálogo que tienen los gobiernos con esos grupos con esos movimientos en fin yo creo que ya es una buena base de diálogo para asentar un acuerdo vamos a decir que

no solo tiene voluntad hacerlo sino que ya lo está haciendo y que va a haber tiempo de discutir de evaluar de corregir

por tanto creo que la responsabilidad de todos es la de trabajar juntos y los resultados indudablemente si se trabaja bien si se trabaja con rigor y con seriedad van a ser beneficiosos

desde luego la más mínima duda la duda que me surge es si el gobierno

de no tener iniciativa de no tener rumbo de no saber por dónde

que el flanco de crítica para la oposición siempre va a estar ahí

qué hubieran dicho ustedes si esa metodología hubiera sido otra y yo creo que la metodología que está siguiendo este gobierno como la que está siguiendo el gobierno de españa es la adecuada

la mayor parte de los discursos que hemos escuchado en la primera intervención por parte de los grupos de la oposición en un porcentaje altísimo se ha destinado

cuál era trabajar los proyectos que tenemos que presentar

o criticar al gobierno esa es la duda que me surge porque si desde luego el objeto

es la de criticar al gobierno mal empezamos mal empezamos y considero que es un error porque el pleno de hoy tiene que ser una oportunidad para sentar las bases tiene que ser un pleno propositivo un pleno proactivo

a ese gobierno ustedes hoy venían a criticar al gobierno no a debatir sobre los proyectos por lo menos hasta ahora y hablo por mí no hablo por otros yo hablo por mí desde luego el tono que se ha utilizado en algunos casos desde luego creo que no contribuye incluso al propio

el acuerdo o por lo menos lo que hoy debemos debatir aquí y creo que es un error porque hemos perdido toda una mañana

para contrastar ideas para contrastar las bases que nos mueven a cada cual los objetivos que consideramos cada uno de los grupos políticos que estamos representados en esta cámara para presentar los proyectos de los que tanto hemos hablado

con bastante más concreción que los grupos de la oposición que tantas ganas tienen de presentar sus proyectos pero que desde luego en la sesión matutina no han dicho

algún grupo incluso que por cierto ahora está ausente de la cámara ha dicho que tiene sesenta y seis propuestas para presentar pues han perdido un tiempo precioso que muy probablemente hoy por la tarde les falte para explicar

de los proyectos y de las propuestas que van a presentar hubiera sido muchísimo más productivo que esos grupos nos hubieran traído ya esas propuestas concretas hoy por la mañana para saber

de qué estamos hablando no cuál es su opinión o su crítica al respecto de la labor que está haciendo este gobierno por tanto yo me gustaría terminar desde luego afirmando que desde la parte socialista de este gobierno desde luego hay plena voluntad de trabajar mano tendida disposición absoluta

al trabajo conjunto y desde luego al trabajo responsable para que los proyectos que presentemos desde luego no solo sean creíbles no solo sean realistas sino que sobre todo

histórica eskerrik asko gracias señor andueza tiene la palabra

eskerrik asko legebiltzarburu jauna señor otero tiran la piedra y luego pretenden esconder la mano si algo orgullosa si salgo orgullosa en defensa de este gobierno y de sus actuaciones es porque una y otra vez

injustificadamente atacado criticado y cuestionado y todo esto es legítimo hacerlo claro que sí pero ustedes lo hacen con maldad

embarrar y desgastar sea con los fondos con la pandemia o con cualquier otro asunto que lo convierten en su batalla política aprendan a pensar más en esta sociedad

defendemos a un gobierno de sus críticas injustas y no ajustadas a la realidad en cualquier caso

el veintiuno de diciembre cuando este gobierno en el consejo de gobierno aprobará su relación de proyectos su primera versión

de la unión europea el proceso por lo tanto no ha terminado ni de lejos podemos ayudar a este gobierno a este país pero no cambiando de arriba abajo

ha sido un proceso abierto participativo consultado han sido muchos los agentes con los que se está

les han oído ustedes a ellos cuestionar este modelo pese a todo sabemos que se puede mejorar todos los grupos podemos aportar pero quiere bildu acordar porque normalmente en este tipo de debates el grupo proponente comparte sus propuestas para facilitar

no ha sido el caso somos una sociedad moderna avanzada

un buen rumbo que nos conducirá si acertamos a superar esta crisis y transformar nuestra sociedad hacia una sociedad más verde

tenemos que acertar y lo haremos si la iniciativa

de euskadi probablemente la socialización hubiera sido diferente pero eso no ha sido así

las ayudas dependen de tres niveles institucionales y son una gran complejidad la estructura de los fondos da la potestad a los estados y posteriormente a las comunidades autónomas para coordinarlas sobre el terreno es la estructura que

el objetivo en este calendario complejo y apretado es que aterricen en euskadi el máximo número de fondos posibles berriz ere guk eajtik

está preparada para aportar su experiencia y poder participar en el desarrollo de estos fondos lo hemos hecho en el pasado con otros programas europeos y lo haremos ahora tenemos posición clara en europa euskadi tiene trayectoria reconocimiento y un sector productivo que está trabajando en proyectos de futuro

más allá del covid nuestros sectores e instituciones se están moviendo y euskadi puede aportar muchos proyectos solventes

los estados miembros son la puerta de entrada a los fondos pero los gobiernos autónomos somos el piloto de esa recuperación pegada a la realidad territorial desde el verano como decía antes el gobierno vasco lleva trabajando en la selección e identificación de proyectos y es vital este trabajo porque sabemos que no sirve cualquier proyecto

transformador ha recibido como también les he dicho antes muchas aportaciones de muchos actores instituciones confederaciones empresariales sindicatos cámaras de comercio entidades financieras cooperativas sociales y laborales y podría seguir

por tanto ya me dirán dónde está la aberrante falta de colaboración y contraste social tal y como se pone hoy aquí de manifiesto pero además el marco conceptual y estratégico definido por el gobierno vasco incorpora las propuestas presentadas entre otros partidos los presentados por eh bildu

por lo tanto les pedimos dejar un lado de esta postura demagógica puesto que se fuera por ustedes estaríamos sin empresas

no hay más que mirar alrededor pero nosotros seguiremos gestionando con rigor con consensos acuerdos y con transparencia como lo hemos hecho hasta ahora

práctica deliberativa y la búsqueda de la eficacia ejecutiva este caso se ha dado con la fórmula de la coordinación interinstitucional hor geratuko naiz eta amaitzeko

especialmente en una situación extremadamente grave como la que estamos viviendo

y si todos queremos avanzar y mirar al futuro con optimismo vamos a trabajar juntos desde una visión propositiva de mejora

el testigo tenemos una enorme oportunidad para levantar una euskadi verde digital y más solidaria una oportunidad para transformarnos como país

no ha habido precedente en europa y debemos estar muy bien posicionados el trabajo que viene desempeñando el gobierno en colaboración con los agentes sociales y económicos

si todos y todas nosotros aportamos nuestras manos nuestra experiencia nuestras reflexiones estaremos ayudando en positivo

en este partido encontrarán una disponibilidad sincera para el acuerdo esperamos encontrarla también en el resto beste barik eskerrik asko

finalizado el turno de intervenciones de los grupos si la información que tengo es correcta

para presentar las resoluciones ante el registro y suspender para reanudar posteriormente el debate según me cuentan esta es la parte de la información todos los grupos tienen ya las

por lo cual parece que treinta minutos a partir de ahora para presentar las resoluciones ante el registro sería suficiente es decir finalizaría a las trece cuarenta y cinco y el pleno se reanudará a las tres y cuarto de acuerdo